alorrari dagokion aldetik el partido popular ha empezado con una crítica de que no ha habido ningún esfuerzo en diez meses reconociendo así lo ha dicho usted señora quiroga la angustia que

el lehendakari haciendo referencia a los proyectos de ley que únicamente ha traído el gobierno vasco a debate al parlamento vasco en este

yo no voy a extenderme en recordar cuáles son los nueve meses y que son nueve meses y qué son que son nueve meses y qué son nueve meses de cuando venimos y por qué estamos como estamos y qué es lo que estamos haciendo pero entrando en lo que

a una reflexión general sobre lo que han sido las intervenciones de cada uno de los representantes de las formaciones políticas con representación parlamentaria usted ha dicho sobre

lo sabe usted perfectamente no me venga usted ahora nueve meses después con todo lo que hay en estos nueve meses que contemplar en lo que es la historia de este gobierno con una apelación a lo que es la tramitación de proyecto de ley ni usted ni algún otro portavoz parlamentario

un programa legislativo como hemos presentado sabe usted que hay un plazo de tiempo que hay que tomarse para tramitar los proyectos de ley a presentar en esta cámara bien las críticas están bien ha empezado usted con la ejecución presupuestaria ha seguido con lo que es el endeudamiento sobre estas cuestiones me detendré luego en la exposición ya

de todo lo que es la acción de gobierno pero hombre en relación a lo que es el endeudamiento no puedo permitirle señora quiroga que me haga usted esta referencia al endeudamiento por parte de este gobierno cuando nos encontramos en una situación de que a diciembre del año pasado diciembre de dos mil doce cuando este gobierno toma posesión nos encontramos con seis mil millónes de euros de deuda

sino que hay que referenciarlo a la deuda que existía cuando empezó su andadura el gobierno vasco anterior que era de seiscientos cuarenta millónes de euros es decir

multiplicó como lo he dicho aquí hasta la saciedad y no quiero volver a hacer lavirada hacia atrás

la deuda que había recibido el gobierno vasco anterior en el inicio de su andadura pero no solamente eso señora quiroga que se multiplicó por nueve

y en todo caso se multiplicó siendo que el partido popular apoyaba al partido socialista de euskadi que era quien tenía la responsabilidad de gobierno señora quiroga

o ha hablado usted del nuevo estatus ha hablado de lo que es el pacto pnv pse en cuanto a los intereses vinculados a los intereses de país o a los intereses propios

que debería ser la que tuviéramos que seguir en la comunidad autónoma del país vasco y cuál es la fiscalidad que se observa en el acuerdo entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco yo creo que es necesario recordarle señora quiroga que no sé realmente

el acuerdo en su integridad y sobre todo en lo que afecta a la parte de la fiscalidad

en el acuerdo suscrito entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi es favorecer la actividad económica

de que el impuesto de sociedades tiene medidas para capitalización de las empresas

potenciando con un tratamiento especial al mantenimiento y a la creación de empleo y le recuerdo que son dos puntos menos sobre la tarifa mínima

fiscal creo señora quiroga o que no se ha leído el acuerdo o que quiere confundir la estimación de una mayor recaudación fiscal o de una recaudación fiscal si de mil quinientos millónes de euros y lo lleva usted a pregunta

se ha insistido también estos días pasados y pregunta usted de dónde salen

también en esa parte de fiscalidad en el acuerdo entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi salen

salen derivados de la reforma fiscal en los próximos tres años y la concreción

de la reforma del impuesto de patrimonio de la reforma del impuesto de sucesiones la concertación de nuevos tributos también de nuevos impuestos y de lucha contra el fraude de ahí es de donde sale señora quiroga y quiero expresarle esta realidad del acuerdo suscrito entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi al margen de lo que es otras consideraciones que también entraré en

mi disposición al diálogo a la que también apelaré por lo que era su disposición también en su intervención el señor

ha hablado de lo que es estar en el gobierno y no es gobernar estar en el gobierno

falso es lo que usted plantea señor lópez falso es decir que el turismo ha decrecido

es verdad si solamente toma unos datos referidos al mes de julio

y es falso porque sigue incrementando el turista extranjero y baja el procedente del estado como sucede en el resto de comunidades autónomas y el resto del estado español y no quiero entrar aquí hablar tampoco de lo que es la especificidad del turismo que será en la comunidad autónoma del país vasco

en el estado español en función de lo que suceda en la parte

señor lópez no vayamos por ahí porque retorcer todos los datos nos lleva a confusiones interesadas

pero hay una cuestión que sí le quiero advertir de entrada también una consideración que usted ha hecho en relación a la mesa de diálogo social como si fuera un fracaso de este gobierno

de los convenios o la firma de convenios y le quiero resaltar que nada tiene que ver lo que pueda ser la mesa de diálogo social con la firma de convenios que tenían que haber existido y que no han existido sobre la reactivación económica simplemente le diré de manera concreta que este gobierno ha habilitado el mayor apoyo económico de la historia a la industria

y me parece que esto es importante destacarlo por sí mismo dentro de lo que es la explicación posterior de lo que ha sido la acción de este gobierno beraz

ha agotado gran parte de su intervención en criticar el acuerdo partido socialista de euskadi partido nacionalista vasco y sabe lo que pienso realmente

ante lo que es la orientación política de este gobierno

lo que a usted realmente le molesta es que se puede quedar fuera de ese pacto

y que quedándose fuera su voto pierda el valor que hasta ahora ha podido tener en estos nueve meses de esta legislatura esto es lo que realmente pienso con esa crítica que ha hecho usted al pacto partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi

sinceramente señor maneiro donde no he visto novedades es en su discurso las mismas frases hechas

las mismas coletillas desde el debate de investidura viernes tras viernes

las mismas frases chiringuitos soledad ponerme de perfil falta de responsabilidad etcétera esas son las cuestiones que usted una y otra vez viene manifestando en sus intervenciones en el parlamento vasco y también en esta sesión de hoy

no necesita recordarme que soy lehendakari nadie necesita recordarme que soy lehendakari y que por lo tanto tengo una responsabilidad sé muy bien porque así la asumí el día trece de diciembre cuando fui votado en esta cámara por los votos del grupo nacionalistas vascos euzko abertzaleak no quiero

ha de recordarme cuál es mi responsabilidad no recordar yo tampoco a nadie cuál es

o no entrar en otras cuestiones en cuanto a lo que usted señor maneiro posiblemente representa en el conjunto de lo que es la política

en estos momentos cuando menos en estos momentos señora quiroga volviendo a lo que ha sido el conjunto de su intervención yo le agradezco mucho su tono aunque no comparta muchas de sus opiniones como he pretendido reflejarle en lo que ha sido sus apelaciones a dos cuestiones que me parecen importantes cuáles son

el endeudamiento de este gobierno y la fiscalidad en cuanto a lo que es el contenido del acuerdo suscrito entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco dicho eso señora quiroga

no puedo aceptar como ejemplo la privatización de la sanidad la reducción de becas y ayudas para educar a la juventud no puedo aceptar

como un modelo de referencia para la comunidad autónoma del país vasco sabe usted señora quiroga que desgraciadamente

serán españoles en europa uno de cada tres pobres en europa serán españoles no vayamos por lo tanto a los modelos de referencia que son fracasados como es el del gobierno del partido popular en el conjunto del estado español repito

el partido popular prometió bajar los impuestos y el resultado es que han subido todos el partido popular prometió bajar los impuestos y qué es lo que ha hecho

de fiscalidad suscrita entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco señora quiroga prometió bajar los impuestos y sigue prometiendo una futura bajada de impuestos mientras los siguen subiendo comprendo por otra parte en lo que ha sido su intervención y en otro bloque

su dolor el de todos y todas las componentes del partido popular con representación en este parlamento y fuera del mismo como también del partido socialista de euskadi particularmente

en este parlamento vasco por lo que han sufrido en el pasado así como también upyd también el partido nacionalista vasco ha sufrido los embates

de una manera no solamente ética personal sino ética colectiva del partido nacionalista vasco comprendo perfectamente lo que es su dolor lo que es el dolor de todas y de cada una de las víctimas ahora bien creo que en el ámbito de la paz y de la convivencia señora quiroga tenemos que avanzar

he hecho referencias concretas a lo que entiendo por la necesidad de memoria verdad justicia y resarcimiento reparación de las víctimas esa es una máxima que tenemos en el conjunto del partido nacionalista vasco

para fundamentar lo que es ese plan de paz y convivencia que insisto está abierto usted ha mostrado su disposición al diálogo y sabe usted señora quiroga y lo sabe y lo ha comprobado que mi disposición también es la misma

y su formación y también con el resto de formaciones pero especialmente también

que tiene y lo reconozco una responsabilidad institucional en un territorio como la tiene bildu también en el territorio de gipuzkoa por lo tanto la disposición que usted ofrece lleve por respuesta también la recíproca por mi parte que creo que ha podido comprobar hasta la fecha señor lópez

en un tono bronco tampoco quiero que se piense que el que uno no utilice tonos broncos signifique que uno es ingenuo

o que deja pasar las cosas así por así pero no quiero entrar en esa dinámica porque ciertamente oyéndole a usted

época y otro momento otro contexto como hoy

parece que la historia del universo y el libro de génesis empiezan con usted o con el partido socialista como parece que empezó con el gobierno del partido socialista y le recuerdo también a usted señor lópez gobierno del partido socialista apoyado por el partido popular

para toda una legislatura contó con una mayoría absoluta sustentada en los votos del partido popular hasta que el partido popular

con alguien a partir de la ruptura con el partido popular asumió usted la disposición a acordar con el partido nacionalista vasco algo no quiero refrescar la memoria pero podría recordarle perfectamente que algunas cuestiones que se están diciendo sobre sostenibilidad en las políticas sociales

una legislatura municipal y foral diferente a la actual y alcanzamos un acuerdo suscrito

entonces hamaikabat y el partido nacionalista vasco y fuimos nosotros

institucional que tenía más apartados que meramente era en aquel momento ya de manera grave la sostenibilidad de las políticas públicas sociales

planteándole por escrito cuáles eran los diez ejes de actuación futura que teníamos que tener en euskadi planteándole cuáles eran las propuestas de actuación cuáles eran las preocupaciones que teníamos en aquel momento como partido nacionalista vasco y cuál era nuestra disposición permítame recordarle señor lópez cuál ha sido nuestra disposición también en relación a medidas para afrontar la crisis de una manera urgente

le ofreció en su momento siendo que usted insisto tenía un gobierno apoyado en el partido popular y contaba con una mayoría absoluta

dicho lo cual no he venido a mirar atrás señor lópez y no voy a entrar en la casuística concreta no voy a mirar atrás hemos firmado un pacto

y le voy a reconocer simplemente una cuestión señor lópez

estamos peor que hace nueve meses y es hoy cuando lo estoy diciendo también

no estamos bien pero le garantizo una cosa le garantizo que lo vamos a dejar mejor de lo que nos encontramos

bien no tengo ningún problema se lo acepto sabe usted cual es la disposición de este que les habla y en estos momentos lehendakari pero no porque sea lehendakari

en mi intervención de esta mañana creo que mi trayectoria es honesta también en esta cuestión yo le pido que lo discutamos en cuanto a lo que pueda ser el modelo de estatus jurídico en la ponencia del parlamento vasco eta

comprometí una nueva forma de gobernar conozco las dificultades de la situación económica desde el primer día lo he afrontado con toda la responsabilidad según se me ha apelado también en las intervenciones de esta tarde no he acudido al recurso fácil de mirar atrás de culpar a los anteriores de las penurias y dificultades del presente más que lo justo y no lo voy a hacer por muchas invitaciones que reciba

está mal he dicho con transparencia absoluta que los ejercicios dos mil trece y dos mil catorce van a ser duros

que nuestra primera labor ha sido parar el golpe de la crisis ordenar la realidad presupuestaria con rigor centrarnos en la garantía de los servicios públicos esenciales

de los gastos corrientes y los servicios externos estamos en un momento crítico afirmo con toda claridad que sin este ejercicio de transparencia y realismo el futuro económico de los servicios públicos podría estar en cuestión

es necesario por lo tanto asumir la realidad poner los pies en el suelo para salir adelante y no creo que sea por un emplazamiento al gobierno o al lehendakari sino porque desde le mismo día del debate de investidura así lo estoy diciendo

en relación a lo que es la acción de gobierno no solamente en lo que es el ejercicio de mi responsabilidad sino lo que es la acción de gobierno soy el primero que reconoce que hoy como he dicho en la intervención de esta mañana hay más necesidades que antes y menos recursos también se ha dicho en la sesión de esta tarde

y quiero subrayar que ante esta situación este gobierno ha respondido son palabras a las que respondo con hechos hecho uno reducción de los altos cargos y el número de departamentos en un veinte por ciento hecho dos control de las cuentas públicas ajustando nuestros gastos

hecho tres plan de choque por el empleo dotado con doscientos cuarenta millónes que contemplan la puesta en marcha de sesenta y cinco iniciativas

hecho cuatro mesa de trabajo institucional con diputaciones y ayuntamientos para invertir

hecho cinco mesa de diálogo con los partidos políticos cuyo fruto inicial ha sido el acuerdo firmado el lunes que compromete un plan de reactivación económica y del empleo

hecho seis puesta en marcha de quinientos becas de internacionalización

y previamente presentado a los líderes de las formaciones políticas con representación parlamentaria hecho ocho

hecho nueve plan de avales de trescientos millónes de euros ampliables a otros trescientos millónes para relanzar la economía de las pymes y mantener los puestos de trabajo

aplicación de un presupuesto social insisto en lo que he dicho en la intervención matinal hemos invertido setenta y seis de cada cien euros en sanidad educación y protección social de ahí es fácil sacar la conclusión de que con mil doscientos millónes de euros menos

o redimensionamientos o periodificaciones o aplazamientos en otros programas el mayor porcentaje que jamás un gobierno haya dedicado a políticas sociales

este gobierno con un presupuesto prorrogado sí pero que se está ejecutando con disciplina presupuestaria esto es lo que el gobierno por ejemplo ha hecho no son palabras son hechos hechos incuestionables me voy a detener un momento en el contenido social de nuestro proyecto

en mi intervención he reconocido las carencias y necesidades presupuestarias no lo ocultamos lo asumimos desde el primer día con responsabilidad el nuevo gobierno

del once por ciento que nunca antes ningún gobierno había afrontado y no vamos a mirar atrás insisto lo asumimos con responsabilidad

solo desde el rigor y el control presupuestario solo desde el realismo vamos a poder superar esta crisis como también se está diciendo en las intervenciones que me han precedido

las conozco bien lo que es innegable es la prioridad del gobierno o que el gobierno ha otorgado a los servicios públicos esenciales de sanidad educación y protección social hemos tenido que hacer ajustes en las inversiones en infraestructuras es cierto pero tan cierto como que el servicio de sanidad se ha preservado

la estructura directiva y para el control del gasto corriente el ajuste ha sido interno para que la calidad del servicio al ciudadano se mantenga me van a permitir aclarar un indicador socialmente muy importante por ejemplo las listas de espera se han reducido en tres días en relación al año pasado

objetivo después de seis meses nos indica que hoy los ciudadanos tienen que esperar tres días menos que el pasado año lo considero un gran logro en las circunstancias

el gobierno ha tomado la iniciativa el gobierno ha tomado la iniciativa lo he dicho

lo he dicho también en la intervención de la mañana vamos a aprobar un decreto de medidas compensatorias de los gastos sanitarios para garantizar la equidad

o interpelaciones sean formulados sobre esta cuestión en el parlamento vasco o en los plenos de control

he apelado al cuidado con el tratamiento de esta cuestión al cuidado con el tratamiento de esta cuestión por lo que es

que nos circunda no solamente en la comunidad autónoma sino en la actividad también jurídica en el contexto del estado español pero dicho lo cual y diciendo que queremos garantizar la equidad de las personas que se encuentran en situación objetiva de enfermedad y con especiales dificultades económicas reitero lo que he dicho esta mañana en mi intervención de lo que ha sido la exposición

reitero es garantizar la equidad en la salud de todas aquellas personas que se encuentran en situación objetiva de enfermedad y con especiales dificultades económicas y he dicho

de estas medidas tendrán una consideración específica las personas jubiladas y pensionistas con ingresos inferiores

y he dicho entre los colectivos destinatarios en plural y no nos quedamos solamente en el colectivo de los pensionistas con una renta inferior

de noviembre probablemente aprobemos desde el departamento de salud el decreto contemplando aquellos colectivos además de las personas que son pensionistas y que tienen una renta inferior a los dieciocho mil euros

colectivos más desfavorecidos como por ejemplo pueden ser

que han perdido todas las posibilidades de prestaciones por esa situación de desempleo por lo tanto en primer lugar vamos a dar una consideración especifica a las personas jubiladas y pensionistas con ingresos inferiores

estas medidas se aprobarán insisto este año pero en todo caso tendrán carácter retroactivo desde el día uno de julio y una cosa que quiero desatacar también en relación a esta cuestión invito a todos los grupos parlamentarios a que analicen

o en la compensación al copago hay alguna otra realidad en el conjunto del estado español que vaya por este camino ni de comunidades autónomas gobernadas por el partido popular ni de comunidades autónomas gobernadas por el

hemos mantenido también nuestro compromiso con la educación esta es una prioridad para el gobierno

las ayudas al transporte y el comedor la dotación de becas hemos mantenido la aportación a los conciertos educativos y este año hemos recuperado las ayudas para la adquisición de libros que el pasado año tuvieron una dotación cero la protección social ha sido también una prioridad de este gobierno se ha criticado la falta de atención a las ayudas de emergencia social y aquí quería

las conocemos bien y es que el gobierno vasco garantiza la protección social lo afirmo con rotundidad

la renta de garantía de ingresos es un derecho subjetivo esto significa que el gobierno garantiza esta protección el pasado año el año dos mil doce fueron cincuenta y nueve mil novecientos las personas quienes estaban recibiendo

este año la están recibiendo sesenta y uno mil quinientos personas

este año en renta de garantía de ingresos que sí son derechos subjetivos

van a tener la garantía de esta protección social esta es la garantía básica este es el compromiso con las personas de este gobierno las ayudas de emergencia social son una ayuda complementaria no son derechos subjetivos son una ayuda complementaria la decisión del gobierno ha sido mantener la cuantía de las aes en los mismos términos que el pasado año y recuerdo el anterior gobierno

que constaba en los presupuestos del año dos mil doce hemos invertido lo mismo en ayudas de emergencia a pesar de contar con mil doscientos millónes menos de presupuesto les diré más

si disponemos de recursos adicionales vamos a priorizar un refuerzo de estas partidas pero insisto en cuanto a lo que son las ayudas de emergencia social son una ayuda complementaria en definitiva si hay más perceptores de renta de garantía de ingresos

ayudas de emergencia social se mantiene por lo tanto es incuestionable que el gobierno vasco está ofreciendo una protección social mayor que el año pasado esto es

paso a lo que son cuestiones que tiene que ver con la orientación política del gobierno con la dirección del gobierno

también es verdad que cuando contraponemos estos hechos concretos a las palabras

también hemos demostrado como gobierno que sabemos a dónde vamos tenemos una estrategia clara que compromete al gobierno en su conjunto una estrategia orientada

con una visión integral e integradora del país nuestras decisiones son la prueba de nuestra estrategia y de nuestras prioridades por ejemplo hemos planteado un programa de gobierno con seiscientos quince iniciativas y eso marca lo que es la estrategia de este gobierno lo hemos hecho público y lo hemos remitido a este parlamento hemos planteado también un programa legislativo que contempla veintinueve nuevas leyes que serán aprobadas a lo largo de la legislatura la presentación de los catorce planes de estratégicos que estructuran

y del crecimiento sostenible el plan de paz y convivencia con dieciocho iniciativas concretas el programa lehen aukera iniciativa pionera en el estado para facilitar una primera experiencia laboral tal y como he referido en la sesión de esta mañana

la estrategia de formación profesional el impulso a la estrategia basque country también

a la consolidación de nuevas junior cooperativas para ayudar al

hemos planteado también un grupo de trabajo para paliar y encauzar el problema del sector naval iniciativas conjuntas que garanticen su viabilidad y el mantenimiento de los empleos

y que acuerda un programa de estímulo para la economía y la generación de empleo por lo tanto creo que pese a las críticas es un gobierno activo y con estrategia y que la sociedad vasca así lo ha de saber he presentado hechos he presentado decisiones he presentado orientación estratégica del gobierno

el gobierno va a seguir atendiendo y respondiendo a las necesidades poniendo en marcha actuaciones durante estos próximos meses el movimiento sí se dice que se demuestra andando

son actuaciones concretas y constatables vamos a plantear la elaboración y desarrollo del marco pedagógico del currículum vasco para la educación básica

para impulsar un programa de microcréditos y facilitar la puesta en marcha de pequeños negocios vamos a plantear la apertura de consultas externas del hospital universitario de araba también como está recogido en el acuerdo suscrito entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco

la apertura del archivo histórico de euskadi como he referido también esta mañana la propuesta interinstitucional para iniciar los trabajos de regeneración de la bahía de pasaia

los tres nuevos centros de salud en sabalgana salburua y portugalete

eskerrik asko legebiltzarburu andrea son además de los hechos son además de la orientación son también actuaciones

son actuaciones concretas a desarrollar este mismo año no durante este año y el que viene sino este mismo año son compromisos de este gobierno que vamos a cumplir

iniciativa se nos reclama y no nos conformamos con la anterior

cuando hablamos del compromiso con las personas estamos haciendo referencia a una nueva forma de gobernar hay quien pretende

o quien pretende que el mundo ha estado parado hasta que ha llegado para darle cuerda hay quien pretende que el mundo también esta parado con este gobierno yo no me voy a detener en debates endógenos y cerrados sobre nuestro propio mundo porque nuestro mundo real como también aquí se ha expresado en la sesión de la tarde en lo que llevamos hasta ahora las personas

y la responsabilidad del gobierno es adoptar iniciativa sí y esto es lo que nos ocupa y esto es en lo que estamos ocupados iniciativas que también vamos a plantear además de los hechos además de la orientación además de las actuaciones

iniciativa de inversión de ciento ochenta millónes de euros con las diputaciones forales en proyectos de modernización y de apoyo a la economía real

de ochocientos noventa viviendas de protección oficial e impulso de la vivienda social en alquiler el plan de residuos de la comunidad la financiación de mil ochocientos sesenta millónes mediante avales a las pymes en tres años el proyecto industrial en el sector de la energía eólica junto a la iniciativa privada y los centros de investigación

para nuestros proyectos empresariales la puesta en marcha de quinientos cincuenta millónes de euros adicionales para apoyar la economía productiva real el diseño y construcción en dos mil catorce de un centro de fabricación avanzada la inversión de mil trescientos millónes en tres años

de futuro o como dice también el acuerdo suscrito entre los dos partidos el pnv y el partido socialista de euskadi conexión a través de una pasante ferroviaria easo lugaritz que posibilite la continuidad y el enlace irun donostia lasarte beraz

y en cuanto a las críticas también en relación a lo que es la estructura de gobierno me voy a referir a esas críticas a la estructura del gobierno y a la estructura institucional de euskadi

pido coherencia política los partidos aquí representados salvo upyd tenemos y hemos tenido responsabilidades ejecutivas de gobierno todos excepto upyd el gobierno anterior tenía más departamentos y una estructura pública y directiva mayor

el primer partido de la oposición realizó una propuesta pública de gobierno vasco con un cincuenta por ciento más de consejeros y consejeras que el gobierno actual esto es eh bildu

directivas en ningún caso he conocido reducciones del veinte por ciento como la que hemos acometido en nuestro gobierno

y quiero dejar constancia de que hay quien exige a los demás lo que no aplica para sí y el gobierno vasco va a afrontar el debate de la arquitectura institucional desde el ejemplo hemos adoptado primero nuestras propias decisiones antes de solicitar nada a los demás he dicho reitero y volveré

en la intervención de esta mañana un tiempo de acuerdos ahora bien no estamos a la espera de los acuerdos euskadi está acordando ya

todas las intervenciones anteriores también han planteado la necesidad de acuerdos

eskatzen ari zaiguna me detengo ya en dos o tres cuestiones puntuales en cuanto a lo que ha sido también alguna de las

el paro el paro es el gran problema social sin duda pero cuando presentamos el plan de empleo el pasado dieciocho de marzo ya anunciamos que no iba a resolver

pretendía tener un efecto paliativo y lo ha tenido pero no nos conformamos con eso el plan se aprobó el dieciocho de marzo

su estado de ejecución es el siguiente primero cincuenta y siete iniciativas en ejecución segundo tres iniciativas diseñadas y en trámite de ejecución tercero

que hoy el noventa y siete por ciento de las iniciativas previstas en ese plan de empleo presentado el dieciocho de marzo están diseñadas o en marcha estas iniciativas tiene un impacto estimado este mismo año

de la interpretación del crecimiento en el desempleo tienen también el impacto destinado a facilitar la creación de dos mil seiscientos nuevos empleos

segundo un total de dos mil cuatrocientos personas va a incorporarse al mercado laboral y mantener su empleo en el sector de la construcción gracias

tercero se han puesto en marcha programas de incentivos a la contratación que van a permitir la contratación de mil nuevas personas que estaban en paro y cuarto se va a mantener

gracias a los programas de avales y apoyo financiero del que se van a beneficiar más

se ha criticado también en algún momento el fondo de financiación el fondo de financiación del circulante para pymes autónomos y profesionales

yo les puedo garantizar que el gobierno ha cursado y aprobado todas las solicitudes de financiación que le han sido remitidas por las sociedades de garantía recíproca todas

de los dos programas de financiación que están abiertos

y otro por el gobierno vigente las entidades financieras con el aval del gobierno han concedido créditos por ciento cuarenta y tres millónes de euros a más de ochocientos empresas

y hoy confirmo que el programa seguirá abierto y nuestro compromiso es dar respuesta a todas las solicitudes que se reciban

además como he dicho esta mañana la puesta en marcha del instituto vasco de finanzas va a permitir reforzar las iniciativas públicas de apoyo a la economía productiva vasca

ezin gara geratu gai honetan materia de paz y convivencia y en este momento histórico

a mi juicio una pregunta además de exigir el desarme y fin definitivo qué es lo más importante creo que tenemos

una sanar bien las heridas abiertas en nuestra sociedad y dos favorecer una normalización de la convivencia son dos tareas muy delicadas

nuestra sociedad está atravesada por varios miles de esas espirales que afectan directamente a pequeños o a grandes grupos de personas por hechos de signo diferente

debemos insisto sanar o ayudar a curar y sanar estas heridas con tacto y con paciencia debemos encauzar poco a poco esas espirales de dolor más allá de los impulsos y más allá de la demagogia hacia un espacio de convivencia y reencuentro social

del plan de paz y convivencia creo que esto es lo importante y sinceramente les digo que mi sensación es que la sociedad vasca en el proceso de paz y convivencia va por delante muy por delante de la política y la sociedad vasca nos está indicando el camino a seguir

del gobierno vasco propone avanzar en este camino recoge insisto entre sus dieciocho iniciativas proyectos que vienen de la anterior legislatura del anterior gobierno y del anterior parlamento este plan es el fruto del diálogo que precedió a este gobierno sí y también al trabajo anterior

es algo que quiero subrayar y poner en valor mañana o pasado mañana mejor dicho se acaba el plazo para recibir aportaciones al plan de paz y convivencia y haremos el máximo esfuerzo para que inquietudes y aspiraciones plurales como se han expresado aquí por parte del partido socialista de euskadi

que se ha referido a la cuestión lo han expresado haremos el máximo

aspiraciones y que tengan cabida en el plan del gobierno vasco buscaremos el diálogo

y buscaremos el acuerdo insisto en lo que he dicho esta mañana el diálogo es la herramienta del plan y el acuerdo es su misión he dicho esta mañana

hauxe dugu horretarako une eta leku egokia legebiltzarra todas las ideas se pueden defender y este es el momento y este es el lugar para hacerlo

hablar de la posibilidad de una reforma constitucional para buscar un nuevo encaje de cataluña con el estado

mi propuesta es que nos sentemos aquí que negociemos que pactemos la constitución y todos los estatutos de autonomía se han reformado todos menos uno

podemos aplazar la cuestión podemos tratar de obviarla u olvidarla podemos hacer como que no existe

podemos tomar la iniciativa y creo que también en este caso la sociedad nos está pidiendo que ofrezcamos soluciones muy gráficamente nos dicen siéntense

es exactamente lo que pido sentémonos aquí aquí en el parlamento y hablemos con el objetivo de llegar a un acuerdo aquí en el parlamento

debemos demostrar altura de miras y voluntad de pacto y estoy convencido de que ahora es posible

que en este curso político se ponga en marcha una ponencia en la que entre todas las sensibilidades políticas conformemos un foro abierto a todas las ideas y a todas las propuestas

vivimos un momento crítico y necesitamos un espíritu constructivo tenemos que sembrar un momento de cambio en la forma de hacer política que se venía

en euskadi se me ha emplazado a definir o a concretar cuál es el planteamiento que yo tengo sobre el nuevo estatus jurídico político de la comunidad autónoma de euskadi

el acuerdo de que este es el foro el parlamento es el lugar en el que cada representación parlamentaria tiene que o puede presentar su iniciativa puede presentar su idea no voy a caer en el riesgo de que queriendo atender un emplazamiento

una iniciativa planteada por el lehendakari pueda ser

ser motivo de enfrentamiento ser motivo de división creo sinceramente también en este caso en el acuerdo todos ustedes saben

cuál es por lo tanto la duda en cuanto a lo que yo pueda aspirar como miembro del partido nacionalista vasco como lehendakari también nacionalista pero siendo que tengo muy consciente o soy muy consciente de que soy el lehendakari de la comunidad autónoma del país vasco soy

y se reconocerá en el partido nacionalista vasco y por lo tanto en mi persona se reconocerá la aspiración a lo que es la adecuación a la realidad presente

políticas institucionales a las que me he referido en la intervención de esta mañana se reconocerá cual es la aspiración a la bilateralidad

la aspiración a una mayor relación con la comunidad foral de navarra desde lo que es el respeto a la comunidad foral de navarra se reconocerá también cuál es la interpretación que tenemos de nuestra necesidad de mayor presencia en el exterior y de una mayor presencia en aquellos lugares donde se adoptan decisiones que afecten a euskadi con una representación propia de la comunidad autónoma del país vasco se reconocerá también que en el partido nacionalista vasco y por lo tanto en mí hay una apuesta clara

del derecho a decidir de manera pactada no sé por lo tanto si se me reconoce como miembro del partido nacionalista vasco cómo no se puede pensar

no tiene un proyecto un proyecto que tiene claro qué es lo que quiere para un nuevo estatus jurídico político para euskadi pero como lehendakari lo que

y hemos planteado en nuestro programa de gobierno y planteé en el programa electoral es la metodología del trabajo el procedimiento por el que deberíamos trabajar

un acuerdo entre diferentes no voy a entrar en lo que son las consideraciones que en el pasado se han hecho por parte de grupos que tienen representación parlamentaria aquí

para hablar de lo que es la vía vasca desde dónde desde la comunidad autónoma

desde lo que otros grupos planteaban la inmutabilidad en cuanto a la imposibilidad de la reforma de la constitución para ahora pasar

o de quienes se tentaban la ropa en el planteamiento también

casar con lo que es la realidad y el año pasado todavía manifestaban que estaban dispuestos a una reforma del estatuto de gernika sin complejos no voy a entrar en lo que son los debates

que hablando de la necesidad de un estatus jurídico político

poner las bases para que se dé ese debate desde el diálogo debatir las propuestas que cada una de las formaciones políticas plantee insisto que también

es el lugar es el espacio he reconocido en cuanto al futuro político

a todos los partidos políticos en torno a una misma mesa mi alegría por la suma de pequeños acuerdos entre instituciones

no son victorias de unos sobre otros el pacto es una victoria de todos el acuerdo es una victoria de todos

mi empeño y compromiso en extenderlo en extenderlo a otras instituciones euskadi está en un momento crítico un momento crítico que requiere asentar nuestros valores he hablado también de la transparencia de la verdad de un nuevo entendimiento y de la concertación

y es en la necesidad de acuerdos de país acuerdos de país para afrontar este momento crítico que estamos viviendo esta es la base común también de las intervenciones que han tenido lugar hasta ahora

un momento de transición en la economía en la convivencia y en el pacto político no es un momento cualquiera de la historia de euskadi erabakitasun hori izango da gure

esan nahi duela los retos por lo tanto

asumo la responsabilidad del gobierno con la agenda de los retos del presente uno la extensión del acuerdo de fiscalidad y lucha contra el fraude dos el acuerdo interinstitucional con las diputaciones forales y eudel tres

para la concertación de los tributos el cupo y el concierto cuatro la aprobación del plan de paz y convivencia cinco la elaboración y presentación del presupuesto para el año dos mil catorce en esta mi última intervención

y el primer reto de euskadi y la prioridad del gobierno es la crisis en este momento tan delicado vamos a seguir conociendo situaciones duras pero convencidos de que vamos a salir adelante de que vamos a salir de la crisis

la clave es hacerlo cuanto antes y habiendo generado las condiciones para garantizar el futuro económico y social de euskadi

el escenario sin eta y sin violencia que estamos viviendo no nos puede llevar a las instituciones a creer que se ha conseguido el objetivo a no actuar

y el tercer reto es alcanzar un marco jurídico compartido para euskadi el gobierno vasco trabajará con este parlamento en buscar

el objetivo es el reconocimiento de euskadi como nación actualizando su marco jurídico tengo la convicción de que estamos en un momento de cambio y que necesitamos espíritu constructivo para afrontar estos retos de país nuestra acción va a ser la clave para el euskadi del futuro tenemos la responsabilidad de asumir el momento